muchas gracias señora presidenta señorías el gobierno vasco aprobó

estratégica del euskera dos mil trece dos mil dieciséis un plan de acción que

era dotado con trescientos treinta y cinco millónes de euros

acelerar la euskaldunización en palabras entonces del lehendakari no voy a entrar en los detalles ya se ocuparon los representantes del gobierno de hacer una presentación pública y también en la propia comisión del parlamento de los detalles de ese plan de esa

por lo menos la polémica el gobierno vasco impulsará el aprendizaje del euskera

y entre otras líneas de acción se prestará especial atención a los adolescentes inmigrantes para que puedan aprender a la lengua vasca atención a la definición

extranjero de la propia consejera en la presentación del plan la consejera fue preguntada por su definición de adolescente inmigrante y su respuesta fue en términos generales se trata de extranjeros provenientes de otros países o también de otras comunidades que no sean la nuestra la comunidad autónoma vasca gente que no es de aquí

esto fue su respuesta se decía y se informó en aquel momento de que efectivamente se iba a informar a ese colectivo de la existencia de ambas lenguas oficiales nos sale cara la información desde luego para que entre comillas se puedan integrar en la sociedad vasca

uno de los retos de este plan

sigue siendo la de repartir dinero público seguir repartiendo dinero público vía subvenciones millónarias

que reciben ingentes cantidades de dinero ese y otros medios

a plataformas y demás chiringuitos cuyo

en esas entidades liberados contratados a dedo etcétera han hecho del euskera un modus vivendi

se trata de mantener con este plan y aumentar las estructuras esos puestos los puestos de todos esos colocados en todas las administraciones ayuntamientos gobierno vasco organismos públicos etcétera comisarios

técnicos del euskera en muchas administraciones cuyo cometido efectivamente es ejercer en muchos casos de talibanes para evitar y tratar de evitar cualquier tipo de discusión o debate en relación con las políticas lingüísticas en nuestra comunidad seguir manteniendo este tema como un tema tabú al que es

o contrario a la lengua vasca bien desvío de fondos públicos

otro de los ejes del propio plan del gobierno en definitiva seguir manteniendo también allí ese entramado esa enorme estructura

aquí y detrás de la frontera también a seaska a las ikastolas privadas de iparralde a ikas bi bigabai

asociaciones cuyos responsables perfectamente organizados además allí además de efectivamente formar parte

trabajan claramente en estrategias ideológicas al servicio del nacionalismo vasco ya no del pnv sino muchos de ellos ya al servicio de las estrategias

hace ya mucho tiempo que el movimiento social del euskera se le fue de las manos está mucho más controlado por los sectores que trabajan día a día en las estrategias organizadas y diseñadas por la izquierda abertzale

trescientos treinta y cinco millónes trescientos treinta y cinco millónes de euros

que no es ninguna broma estamos hablando de cincuenta y seis mil millónes

no es una cifra menor en un contexto como el que vivimos no es una cifra menor en un contexto de crisis de recortes presupuestarios que afectan a políticas básicas

que el gobierno nacionalista desvié a este plan esa ingente cantidad de recursos públicos al tiempo que desatiende necesidades en educación y sanidad

que los sectores productivos necesitan para la generación de empleo podría empezar con algunos detalles en relación con la sanidad aunque me quiero centrar en los

para el euskera pero en sanidad se ha recortado en las inversiones estratégicas se han ralentizado las inversiones por ejemplo ya que estamos en vitoria

las inversiones se retrasan la puesta en marcha de los proyectos y de los compromisos adquiridos se recorta en personal

en más de una ocasión se recortan todas las políticas que tienen que ver con la prevención y la promoción de la salud todas ellas se han visto mermadas

en vez de reforzarlas se escatima recursos en investigación se recortan las inversiones en material sanitario

ejemplos que nosotros hemos puesto ya en otros debates en relación con la sanidad si queremos mantener niveles de calidad desde luego estamos haciendo justo lo contrario pero centrándonos en educación en estos dos años qué ha pasado

vasco el gobierno de urkullu ha recortado de manera grave las partidas presupuestarias destinadas a las inversiones en centros educativos a la construcción de nuevos centros públicos especialmente necesarios en los nuevos barrios reclamados por plataformas de padres creadas en los últimos tiempos en los últimos años

en centros públicos se han paralizado y retrasado las obras de mejora necesarias en muchas escuelas públicas que se encuentran en malas condiciones pero al parecer está no es la prioridad

el plan de infraestructuras dos mil catorce dos mil dieciocho está dotado de doscientos cincuenta y cuatro millónes para cinco años el anterior dos mil ocho dos mil doce

la dotación para obras en centros públicos educativos se han recortado también las subvenciones a los ayuntamientos para la mejora de los centros educativos de titularidad

en un recorte de un cuarenta por ciento se escatiman los medios en la educación para las personas adultas los centros de epa lo hemos denunciado también aquí recortes encubiertos los profesores denuncian disminución en las plantillas etcétera tampoco ellos parecen ser la prioridad de este gobierno se recortan también en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales cuyas familias

denunciando que se reducen los apoyos específicos especialistas de pedagogía terapéutica fisioterapia

denuncian que se reducen los puestos de profesorado de apoyo y les preocupa por supuesto la caída en la calidad del servicio pero tampoco

educativas especiales son la prioridad de este gobierno niegan la gratuidad de los libros de texto retrasando la implantación del sistema de prestamo de libros por falta de recursos puesto que no se están cumpliendo los compromisos del plan acordado para la implantación del sistema de prestamos en todas las etapas del sistema educativo

infantil primaria y la eso y desde luego niegan la oportunidad

al cincuenta por ciento de las familias vascas que llevan a sus hijos a centros concertados recortan en la financiación del ciclo cero tres

sabiendo que las cuotas de las escuelas infantiles suponen en este momento una carga enorme una carga grave para las familias pero tampoco esto efectivamente está

la apuesta necesaria por el inglés y además también

en formación profesional las inversiones en equipamiento en la fp concertada se han visto reducidas en estos dos años también

parece que tampoco la formación profesional forma parte de las prioridades del gobierno

no lo décimos solo nosotros y me gustaría explicar hoy aquí puesto que hay una enmienda de transacción firmada por los grupos nacionalistas y el partido socialista que esto no lo décimos solo

la líder del partido socialista criticó desde el primer momento la orientación y el contenido la atención de la agenda

y lo denunció públicamente idoia mendia porque decía ella confunde las prioridades de la sociedad vasca

de lo que es o no es ser vasco en nuestra comunidad criticó también las cifras idoia mendia salió públicamente a denunciar rechazando que se reserven más de trescientos treinta y cinco millónes a acelerar como se dijo entonces a acelerar las políticas de euskera mientras que se destinaban solo se destinan en el mismo periodo cuarenta y nueve millónes a planes de empleo

que efectivamente se refería a los planes de empleo locales y comarcales que

esa dilación en los retrasos de los planes de empleo que especialmente

de cuarenta y cinco años la realidad es que el gobierno nacionalista va a destinar a la lucha directa contra el paro siete veces menos dinero que el que reserva a la promoción del euskera eso lo decía la líder socialista hace poco meses

no está reclamando ni viene a reclamar hoy una retirada de la agenda del euskera no estamos hablando que se supriman las ayudas a la promoción del euskera queremos que se revise se replantee se haga un replanteamiento que efectivamente el gobierno retire el plan

no es ambicioso porque cae en los mismos errores repite aquellos errores que nos han llevado al fracaso en muchas de las acciones en favor del euskera repite errores y es muy poco ambicioso centra

las administraciones públicas pueden tomar medidas sin necesitar sin necesitar la ingente cantidad de recursos públicos que este plan lleva aparejado un ajuste acciones y un esfuerzo presupuestario creo que es

se necesita en este momento creemos que es el momento de buscar un consenso entre todas las fuerzas políticas para saber hacia dónde queremos avanzar si efectivamente hay algo que objetar sobre lo que se ha hecho estos años

vascos que en los últimos treinta años han aprendido el euskera que contrastan con la cifra que han decidido usarlo de manera habitual

si hay alguna autocrítica que hacer en las políticas lingüísticas del gobierno vasco o si efectivamente se quieren repetir los mismos errores si esto va a seguir siendo

se dedican se desvían ingentes cantidades de dinero de fondos públicos

delos que alguien tiene que dar cuenta y alguien se tiene que responsabilizar desde luego nosotros pensamos que quienes han sido responsables de las políticas del euskera en estos años

o merecía después del esfuerzo realizado el esfuerzo público el esfuerzo social realizado ha sido ingente y creemos que es necesaria una reflexión y desde luego avanzar con un consenso mayor sobre todo repasar cuáles son las prioridades

en este momento y decidir si efectivamente hoy nos podemos permitir esto mientras estamos recortando y racaneando recursos públicos a políticas
y a servicios públicos básicos nada más y muchas gracias eskerrik asko oyarzabal jauna

sí gracias presidenta buenas tardes a todas y a todos nosotros sí vamos a respaldar la iniciativa planteada

partido popular estamos de acuerdo con lo que se plantea en la justificación y también con lo que se plantea en la parte propositiva eso sí nosotros hemos planteado una enmienda de adicción que espero también pueda ser votada al menos por el grupo popular

que se han dedicado al impulso del euskera durante los últimos años y a las cantidades que este gobierno piensa dedicar para los próximos años sino que también

a las políticas lingüísticas que se han aplicado en euskadi durante los últimos años durante las últimas décadas y por esto proponemos esa enmienda de adicción por lo tanto el partido popular únicamente planteaba o hacía referencia a las cantidades

en la agenda estratégica del euskera nosotros hemos querido completarla con

contundente a las políticas lingüísticas que se han venido aplicando en euskadi políticas lingüísticas abusivas y claramente discriminatorias que han perjudicado la vida de miles y miles de ciudadanos vascos dicho esto sí que quiero

la justificación de la iniciativa planteada por el partido popular me trae

que el partido popular hable de manera insistente en relación a los recortes sociales que ciertamente ha impulsado el gobierno vasco porque el partido popular lo sabemos todos es el campeón de los recortes sociales allí donde gobierna y especialmente en los últimos años los recortes impulsados

innumerables tanto en el ámbito educativo como en el ámbito sanitario

o en la protección social y todo esto mientras se han mantenido gastos absolutamente absurdos como puede ser el mantenimiento del estado autonómico

las miles de empresas públicas que siguen sin cerrarse la grasa de la administración

del senado que permiten que personas que perfectamente pueden entenderse

no entenderse y tener que contratar unos pinganillos que son absolutamente prescindibles

con dinero público de las cajas de ahorros que ustedes los señores del partido popular con la ayuda del partido socialista previamente hundieron

esto a pesar de que ya digo que compartimos la iniciativa sí que quería decirlo esta primera sorpresa que me causa la insistencia del partido popular en los recortes impulsados por el gobierno vasco y hay una segunda sorpresa y es que

que el gobierno vasco vaya a destinar trescientos treinta y cinco millónes en tres años para promocionar el euskera porque lo cierto es que el gobierno vasco lleva destinando

décadas por lo tanto me sorprende que a usted le sorprenda esto es decir que digamos que es una política lingüística y de destino de los recursos públicos en cierta forma continuista se mantiene lo que se ha hechoen el pasado y si no podemos observar

al impulso del euskera durante las últimas décadas

se dedicaron algo más de tres millónes de euros en mil novecientos ochenta y cuatro algo más de cinco millónes de euros en mil novecientos ochenta y cinco casi diez millónes de euros en el año mil novecientos ochenta y seis más de doce millónes de euros en mil novecientos ochenta y siete más de catorce millónes de euros en mil novecientos ochenta y ocho más de quince millónes de euros en mil novecientos ochenta y nueve casi veinte millónes de euros

más de veintitrés millónes de euros en mil novecientos noventa y uno casi veintinueve millónes de euros en mil novecientos noventa y dos casi treinta y cinco millónes de euros

en mil novecientos noventa y cuatro casi cincuenta y cinco millónes de euros en mil novecientos noventa y cinco casi sesenta millónes de euros en mil novecientos noventa y seis sesenta y ocho en mil novecientos noventa y siete setenta

en mil novecientos noventa y nueve setenta y ocho en el año dos mil

en el año dos mil uno más de noventa millónes de euros en el año dos mil dos más de ochenta millónes de euros en el año dos mil tres más de ochenta millónes de euros

en el año dos mil cinco ochenta y seis millónes de euros en el año dos mil seis ciento seis millónes de euros en el año dos mil siete ciento nueve millónes de euros

en el año dos mil nueve ciento trece millónes de euros en el año dos mil diez ya con el gobierno socialista solo ciento seis millónes de euros en el año dos mil once cien millónes de euros ya estábamos en plena crisis en el año dos mil doce noventa y tres millónes de euros en el año dos mil trece y el año dos mil catorce cantidades semejantes todo esto suma nada más y nada menos que

y solamente se recogen aquí las cantidades aportadas por el gobierno vasco es decir quedarían fuera las diputaciones forales y los ayuntamientos

en los últimos treinta años todo esto sin contar las aportaciones realizadas por las diputaciones forales

harritzen duela por lo tanto se mantiene lo que se ha venido haciendo durante las últimas décadas se mantiene se mantiene básicamente lo que se ha hecho y lo que se ha venido apoyando por la mayoría de los grupos de esta cámara ingentes cantidades de dinero público sin ningún tipo de control destinadas al impulso y al fomento del euskera con los resultados que todos conocemos prácticamente

que hablaba hace quince o veinte años analicemos en todo caso qué es la agenda bien la agenda estratégica del euskera es el plan del gobierno para

y la mejora de la calidad comunicativa del euskera digamos que estos son sus objetivos incentivar el uso del euskera entre quienes ya saben euskera fuera del mundo de la escuela

la lengua tiene por lo tanto una serie de objetivos y para alcanzar esos objetivos plantean una serie de acciones esto es importante la agenda estratégica del euskera

en el documento euskera veintiuno hacia un pacto renovado y en el esep es decir el plan de acción para la promoción de euskera

porque el documento euskera veintiuno se debatió en este parlamento hace algunos años y solamente upyd votó en contra de lo que se planteaba en ese documento documento euskera veintiuno y en relación

pudo ser debatido en comisión parlamentaria hace algunos meses y solamente upyd votó en contra de este plan de acción para la promoción

realidad por lo tanto yo pido coherencia a todos los grupos señor oyarzabal con todo

usted decía lo siguiente cuando se debatió este plan de acción para la promoción del euskera recientemente antes del verano hace algunos meses usted decía tenemos que poner en valor que compartimos del plan usted decía yo me quiero quedar con el empeño por el consenso que ha manifestado el señor bastarrika cuando ya sabíamos que era lo que se había hecho hasta entonces y lo que ya se sabía perfectamente qué era lo que se pretendía hacer

mesedez decía en aquel debate cuando debatíamos este documento está claro que nosotros hoy respaldamos

esto es lo que decía usted en la comisión hace algunos meses aquí está la transcripción finalmente no votaron en contra se abstuvieron y creo que lo hicieron porque nosotros anunciamos contrario hace algunos meses también en mayo se daba a conocer la estadística sobre los presupuestos y recursos públicos del euskera y se decía que el país vasco dedica al menos ciento cuarenta y seis millónes y setecientos quince funcionarios a fomentar el euskera datos relativos al ejercicio dos mil doce

invirtieron en dos mil doce gobierno socialista en la promoción del euskera al menos ciento cuarenta y seis coma tres millónes de euros más de veinticuatro mil trescientos millónes de pesetas

para servicios sociales al programa de vivienda del ejecutivo autonómico o a un tercio del coste anual de la renta de garantía de ingresos lo concerniente al gobierno vasco se ceñía a casi noventa y cuatro millónes de euros

solo el portavoz de upyd criticó ayer estas cantidades extraordinarias y absolutamente excesivas que a su juicio resultan inaceptables para los ciudadanos quée era lo que decía el representante del partido popular el señor carmelo barrio que no era momento de calificar si esos ciento cuarenta y seis millónes suponen mucho o poco esto es lo que se dijo por parte del partido popular

respaldamos la iniciativa planteada por el partido popular compartimos lo que ha dicho el señor oyarzabal son unas cantidades estratosféricas son unas cantidades

no ha habido control sobre lo que se ha hecho en el fomento del euskera en los últimos años y en el futuro seguramente vaya a ser lo mismo por lo tanto se producen recortes en el ámbito educativo se producen recortes en el ámbito sanitario y se producen recortes en el gasto

cantidades de dinero al impulso del euskera estamos radicalmente en contra por lo tanto de lo que se plantea en esta transaccional ciertamente vista la transaccional visto quienes han firmado esa transaccional vista la enmienda del grupo socialista que ha sido retirada para firmar esta transaccional escuchadas también las declaraciones de la señora mendia criticando la agenda

solamente podemos concluir tristemente que el partido socialista se ha rendido nuevamente a los intereses del nacionalismo vasco
eskerrik asko maneiro jauna triste pero cierto en todo caso nosotros no nos rendimos

ondo ulertzeko zein ondorio daukan bere aplikazioak porque es imprescindible entender que la agenda estratégica del euskera no es

un plan está arbitrado como se tramita el gobierno no es un plan

ni tiene una financiación específica se llama agenda porque es esencialmente la aplicación operativa

para el fomento del euskera que se aprobó en dos mil doce ratificó en dos mil trece y que lo hizo suyo este parlamento en septiembre de dos mil trece esta agenda esta agenda

hemos trabajado en este parlamento dice que la agenda estratégica del euskera reúne en esencia

al gobierno vasco no incorpora siquiera las otras administraciones porque caen fuera del alcance del gobierno y es importante centrar esto

estamos hablando de un plan ex novo con una financiación desproporcionada que es un plan que tiene una casuística que

es menos en cuantía quiero decir en financiación eso es lo que manejamos hoy y por cierto cuando se aprobó el esep y quiero mantener el tono que le agradezco señor oyarzabal la intervención de análisis cada uno de su postura

no presentaron ninguna resolución relativa al gasto ninguna y esto es la concreción operativa

gasto no es nuevo aquí en la página setenta y ocho de esta agenda

la relación de costes y tomando para el dos mil catorce da un total de ciento once coma ocho

euskaldunización en la educación unidades de euskera ivap como ve todas cosas nuevas y además si compara los presupuestos sin más financiación

de justicia es decir lo que hace esto es recopilar los planes que llevan años en funcionamiento y lo que es nuevo proviene del planteamiento de euskera veintiuno y la concreta de un plan el esep

con resoluciones y se trae a una agenda que este gobierno ha querido hacer de una forma operativa

cómo se trabaja en la administración general de la comunidad

podían haberlo traído y hubiera sido siendo igual y no hubiera cambiado nada de lo que había que podemos cambiarlo sí

en otros términos es decir es ver qué cuestiones

o de incorporar nuevas o de reducir gastos o de reubicar en otro sentido y es coger algo concreto tratarlo con seriedad y nosotros

cuando se traiga un tema el problema es que aquí viene una iniciativa que es como un cañonazo contra nada contra el horizonte que dice retírese la agenda sí sí dice eso la agenda perdón la iniciativa dice retirar el plan de medidas denominado agenda estratégica del euskera claro es que es retirar toda la política lingüística del gobierno

es que hay que cambiar todo absolutamente todo es un trabajo para una ponencia de años de más de una legislatura si es que hay que revisar cuestiones centrales que hay programas

hay estos asuntos que discutir y lo discutimos

la consejería de medioambiente pues no pues habrá medidas que estén bien y medidas

es decir es que es una iniciativa que perdóneme pero llama más a titular que a trabajo para modificar algo para mejorarlo

de un sitio para poner en otro no simplemente

por qué razón cuando se habla de políticas públicas sociales se quita del euskera y no se dice vamos a ver cómo reorganizamos el presupuesto como se hace el presupuesto en las enmiendas

para llegar a algo que parece importante por qué razón se quita

socialmente y sin embargo no se va a otras consejerías que también pueden tener alguna cosa que igual no le parece bien o

por qué si lo que queremos es favorecer la lucha contra el desempleo

no vemos cómo repasar el presupuesto para llevar dinero y solo

delictiva a mí no me lo parece me parece que ese planteamiento

analizar mejorar reubicar fondos es necesario siempre pero yo creo que hay que afinar el tiro para no caer en exageraciones y mire nosotros sí priorizamos la lucha contra el paro no retóricamente

se ha explicado antes a la señora mendia cuando hizo una comparación

para indicar la necesidad de que las políticas de luchas contra el desempleo que este gobierno tenía ralentizadas y de los planes comarcales de empleo

en esto se aplican pero esto lo tienen paralizado y es prioritario para los socialistas la lucha contra el paro actívenlo

del euskera sino que esos planes que estaban medio dormidos a lo largo del año

y después de eso solo dos meses y poco más después hemos logrado hablando que es como se resuelven estas cosas con el partido nacionalista vasco y de los cuatrocientos cincuenta millónes de más que se han recaudado

de la parte que toca al gobierno ciento cincuenta millónes se han orientado ya para la lucha contra el desempleo para la educación para

lo mismo en la sanidad y para políticas sociales eso sí es hacer política social luchar de forma efectiva por las políticas públicas y contra el desempleo

no con planteamientos genéricos que lo único que hacen es inducir

de resolver los problemas y yo hoy no quiero dedicarle más tiempo a esto porque quería explicar que nos estamos moviendo en algo que ha habido siempre que no tiene más dinero ahora que ahora mismo está dedicando menos dinero que haces

y que esos planes existían todos y que

cuestiones en cualquier área nosotros creemos que eso no esta mal que hay que analizar pero que hay que hacer propuestas concretas decir dónde está el problema

y lo abordamos pero la cuestión genérica a estas alturas de lo que uno no ha criticado nunca incluso ha apoyado

tratar de borrarlo de golpe simplemente

no parece muy adecuado para defender las políticas públicas sociales y la lucha contra el desempleo cosa que nosotros en esta legislatura gracias a nosotros está teniendo un impulso

los parlamentarios que hayan entrado tarde a la cámara señor oyarzabal estarán pensando que es otra la

cuando han entrado porque ha invertido la mayoría de su intervención para hablar de otras cosas y no del tema que curiosamente usted ha traído a debate y

que se ha hecho en este país desde años atrás ha sido realizada con un gran consenso social y a día de hoy si cabe es mayor simplemente eso

muchas gracias señora presidenta señor reyes efectivamente esto no es un plan es una agenda que no se votó señor maneiro esta agenda no se votó

me quiero referir primero al partido socialista mire es que para justificar su incoherencia ahora nos vienen a decir que esta agenda estratégica no

no supone nada ninguna novedad no aporta nada exactamente el discurso de bildu

muy bien ahora es la nada en junio la señora mendia decía que sí era algo y era la señora mendia la que decía que se aumentaban las partidas un veintiséis por ciento le he dado las cifras anuales

millónes de euros en tres años supone una media de ciento diecisiete millónes de euros pero

haya un aumento de las partidas en palabras de la señora mendia que no se lo inventó sino que era

allá por el mes de junio se aumentaban las partidas de promoción del euskera un veintiséis por ciento mientras se reducen otras

sí se reducen determinadas partidas aquí se aumentan no es que se haya mantenido el mismo montante económico no se aumentan las partidas señor reyes

y además el leitmotiv de esta agenda de este plan que presentó el gobierno eran las cifras porque se querían poner una medalla

mundo para decir a ver quién es más machote en defensa del euskera mire señor maneiro usted equivoca siempre el discurso porque

porque usted aquí ha venido a hacer oposición al partido popular mire hablándonos nos ha tratado de explicar

en aquellos años nosotros criticábamos esas políticas podría haber sacado exactamente los debates presupuestarios las enmiendas del partido popular año tras año yo llevo aquí muchos años enmendando las políticas lingüísticas de este gobierno

que critica pero por supuesto no lo critica todo oiga a usted le parece mal que yo diga que hay cosas de la política lingüística y de los planes del euskera y de la agenda estratégica que me parecen bien es que hay muchas cosas que me parecen bien lo ilógico es que a usted le parezca todo bien a mí hay cosas que me parece bien y lo digo y que me afee

mi apelación al acuerdo me parece absolutamente ridículo pero en todo caso es que durante aquellos años

que votaba a favor de todas esas políticas entonces seguramente no estaba atento a lo que hacía el partido popular en esta cámara y señor isasi

y usted mencionaba a no sé qué del borbón mire sí desde luego yo me siento heredero de aquellos vascos que defendieron a los borbones liberales a los que traían la libertad no como ustedes que son herederos de justo aquellos que defendían a los borbones del absolutismo

a los defensores del machismo y de la falta de libertad en nuestro país a los borbones que defendían el catequismo en nuestro país esos son de los que ustedes son herederos sí

era por mayoría absoluta donde gobernaban entonces aquellos que defendían a los borbones más carcas del momento aquellos que defendían

yo defiendo a los vascos que en aquel momento apostaban por las libertades y por los borbones liberales pero mire dejémonos de historias porque yo aquí he traído un debate que me parece que es muy importante que tengamos en cuenta el crecimiento y conocimiento del euskera en los últimos treinta años

hoy saben euskera no lo sabían entonces y ese es un avance muy importante un gran salto preferido de un gran esfuerzo que ha hecho esta sociedad pero miren el crecimiento en el uso

han decidido usarlo de manera habitual en la última década según datos del propio gobierno solo hemos pasado

ha crecido el uso en la última década justo la década marcada por las políticas de ibarretxe y los presupuestos que pactaban

dinero a expuestas para las plataformas y las estructuras que se llaman

se ha desviado a esas plataformas y esas políticas del euskera es los años en los que menos ha crecido el uso puesto que me preguntaba qué propone qué propone usted

mi propuesta la primera hay muchas otras que hacer pero la primera propuesta es que dejen ustedes especialmente ustedes

de instrumentalizar el euskera mi primera propuesta sería que ustedes dejen de manosear la lengua nuestra lengua que es la de todos que dejen de utilizarla como un trasto

a la cabeza a los que no pensamos como ustedes eso es lo primero que tendrían que hacer ustedes
nuestra primera propuesta es que dejen de politizarlo y de instrumentalizarlo al servicio de estrategias políticas eskerrik asko oyarzabal jauna

sí gracias presidenta no señor oyarzabal no era mi pretensión hacer oposición al partido popular pero sí que he querido criticarle un poco y he analizado

recogía en esa justificación y algunos de los asuntos que han sido debatidos en este parlamento porque yo me he encontrado en este parlamento algunas veces demasiado solo para defender depende qué

al documento de euskera veintiuno yo recuerdo perfectamente aquel debate hace algunos años en el que me quedé solo y yo recuerdo hace algunos meses cuando se debatió el esep hace algunos meses en comisión me quedé solo votando en contra

se abstuvieron y dijeron que compartía los objetivos y que en principio el plan

que me llama la atención que el partido popular hable de recortes porque el partido popular en el gobierno de españa no ha hecho otra cosa más que recortar y ha impulsado recorte sobre recorte

y yo he querido recordárselo y también le he dicho que me sorprende que usted se sorprenda de lo que este gobierno tiene pensado gastar

porque se lo han dicho otros portavoces esto es lo que se ha venido haciendo durante los últimos años durante las últimas décadas no hay excesiva novedad en la materia

hasta ahora por ejemplo en el trienio que va del año dos mil diez al año dos mil doce que ustedes apoyaron los presupuestos del gobierno socialista

más de trescientos millónes de euros y ustedes aprobaron esos presupuestos esto es lo que se ha venido haciendo y esto yo se lo he querido recordar

y es un debate interesante estamos hablando de los dineros que se han dedicado al fomento y al uso del euskera

de analizar qué es efectivamente lo que se ha hecho y cuánto se ha destinado porque es dinero público y estamos hablando de más de dos mil millónes de euros dedicados en los últimos treinta años

con los resultados que todos conocemos unos resultados bastante limitados si los analizamos bien

y a nosotros efectivamente nos parecen unas cantidades que son excesivas que son estratosféricas que son extraordinarias porque el dinero público no es limitado si fuera ilimitado se podría dedicar al

todo lo que ustedes y nosotros quisiéramos no habría ningún problema el problema es que el dinero público es limitado y si se dedica a una cosa no se dedica a otra

al uso y fomento del euskera pues se ha lastrado contundentemente y claramente el estado del bienestar

de la sanidad de las ayudas sociales para destinarlo al euskera y esto hay que analizarlo y a nosotros nos parecen cantidades excesivas y por eso vamos a votar a favor de la iniciativa planteada por el partido popular es que para ustedes todo es poco

cuánto cuánto no hay límite no hay límite

que no hay dinero para las ayudas de emergencia social que determinados recortes no ha habido otra opción que impulsarlos este año y el anterior

por lo tanto las analizamos y a nosotros nos parecen absolutamente

décimos odio ninguno señor isasi rigor sí rigor en el uso del dinero público qué se ha hecho durante tantos años

tanta cantidad de dinero para el uso y el fomento del euskera cuáles son los resultados esto es lo que hay que analizar y ese debate está pendiente en este parlamento porque se lamina al que piensa que este debate hay que impulsarlo

se le llama enemigo de los euskaldunes se nos insulta por plantear que se ha destinado muchísimo dinero al fomento del euskera muchísimo dinero y tenemos todo el derecho del mundo a plantear este debate cuánto dinero pues bien por fin hemos sabido cuánto dinero se ha destinado gracias a una iniciativa parlamentaria de upyd planteada hace un año cuando planteamos una propuesta de resolución

lo que han destinado diputaciones forales y ayuntamientos sobre esto se puede hablar sobre esto se puede reflexionar el dinero público no es ilimitado si se destina a esto tanto no se destina al empleo no se destina

a las ayudas sociales y para nosotros todo eso es lo prioritario la sanidad la educación el gasto social la creación de empleo y por esto

la iniciativa planteada por el partido popular gracias eskerrik asko maneiro jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria reyes jauna zurea da hitza

oyarzabal yo no he dicho que la agenda no suponga nada he dicho que es lo que ya había lo cual es completamente cierto por eso le he leído la página en la que estaba cada uno de los programas con su financiación es lo que había no es que no suponga nada supone lo que suponía

y esto que ya había a usted no le parecía mal por lo tanto incoherencia

corrigiendo lo que muchas veces ha defendido

y sin embargo quiere retirarlo todo lo cual no lo puedo entender sobretodo cuando en las resoluciones que presentó

cuando se votó una de ellas simplemente hablaba de favorecer el incremento de las relaciones en euskera en diferentes ámbitos su uso social

esto no cuesta dinero esto lo ha criticado usted en su intervención inicial

otra propuesta suya que votamos todos a favor con unanimidad decía que

en las relaciones con la administración facilitando que cualquier persona pueda

en esto estamos todos desde hace muchos años y eso no cuesta dinero

del euskera eso no cuesta dinero es verdad que hay que ver

es verdad que hay que ver si algún programa hay que revisarlo

y decir esto ahora necesita menos dinero pero igual esto otro que yo quiero

habrá que revisarlo y quiero hacerle una pregunta que no me ha respondido por qué solo quita del euskera porque los socialistas cuando queremos y queremos constantemente

luchar contra el paro y favorecer las políticas sociales públicas de educación

sanidad y políticas sociales lo que hacemos es allegar dinero para esas políticas orientar el proyecto del gobierno para que vaya a esas políticas

y sin que lata en el substrato de la propuesta esa contradicción suya

de contraponer el euskera del cual dice que hay consenso que usted participa del consenso con las políticas sociales públicas

y a lo mejor estamos de acuerdo pero lo que no puede hacer es decir que se retire todas las actuaciones del gobierno que viene usted durante años sin criticar que tiene resoluciones en el esep que abogan por algunos aspectos nucleares de esas propuestas y luego resulta que no

pero claro las cosas se dicen cuando hay que decirlas por derecho y no vale luego arreglos mire para acabar le voy a leer solo un trozo ya que ha citado usted tanto a la señora mendia y en aquella ocasión la señora mendia dijo

del euskera ajustada al contexto y la realidad del país

no significa pedir que se retire todo lo que durante años se ha hecho en el euskera que revisar pero lo demás es entrar en un terreno de revisión encubierta de consensos que nos han traído muy lejos y muy bien

las cosas la eficacia de los procedimientos eso es lo que hay que hacer pero hombre que se retire todo lo que hay

el euskera no hace una aportación a la cohesión social la valoración de esa aportación tanto en valor social como económico no es acaso muy superior al de muchas otras cuestiones que ustedes establecen como prioritarias

el valor del euskera es enorme y así lo ha reconocido y lo reconoce la sociedad vasca a ver si aciertan dónde he oído estas palabras

y un prometedor futuro a la vista los hablantes debemos defender nuestra lengua sin ningún tipo de complejo y la debemos utilizar en todos los ámbitos de nuestra vida

porque gracias a nuestra lengua compartimos emociones conocimiento y vivencias

pero a nosotros nos corresponde cuidarla reforzarla y extenderla hitz horiekin hasten zen aste honetan irakurri dudan artikulu bat eta bai

implementación del acuerdo adoptado por el gobierno vasco sobre incorporación de criterios sociales ambientales y otras políticas públicas en la contratación de la administración de la comunidad autónoma y

queremos en primer lugar llamar la atención sobre el incumplimiento que el propio gobierno vasco esta haciendo de su propio acuerdo su cumplimiento supondría incrementar considerablemente las oportunidades de mercado para las empresas de inserción así como para la contratación por estas u otras empresas ordinarias de personas desempleadas y en situación de exclusión social

una cantidad económica dedicada a reservas de mercado o la inclusión de determinadas cláusulas socialesen las diferentes fases del procedimiento de contratación

en todas las adjudicaciones por lo menos al veinte por ciento de personas

o sino subcontratar un cinco por ciento del contrato con empresas de inserción sociolaboral eta

cumpla lo que se le pide gracias eskerrik asko maneiro jauna

gracias señora presidenta buenas tardes a todos la verdad es que el tema

en muchas ocasiones y desde distintos aspectos pero lo que es

la inclusión de cláusulas sociales pues las hemos tratado pero creemos que es importante volver a poner de manifiesto una cosa que ha dicho la señora

la posibilidad que tiene la administración de utilizar la introducción de cláusulas sociales como un instrumento para el cumplimiento

que puedan tener especiales dificultades porque mediante ese uso inteligente de la contratación pública pues pueden darse impulsos a políticas activas de empleo e inclusión sociolaboral mucho

a través de un pleno monográfico de empleo de las cifras de desempleo que existen y creo que un instrumento precisamente para conseguir esa inclusión laboral

la introducción de cláusulas sociales porque la contratación puede ser una técnica para conseguir esos objetivos la verdad es que

en distintas instituciones y distintos estadios por ejemplo el parlamento europeo

y supuso un gran avance en materia de cláusulas sociales despejando muchas dudas y abriendo nuevas posibilidades también dentro

desarrollado por el real decreto legislativo tres barra dos mil once también contiene

pública pero no solamente a estos niveles sino también a nivel

en la iniciativa objeto de debate la resolución seis barra dos mil ocho de dos de junio

de la comunidad autónoma y de su sector público pues bien en dicho resolución lo que se hacía referencia

y en el que se aprobó una proposición no de ley precisamente para conseguir este objetivo para incluir las cláusulas sociales en la contratación y en esa proposición se instaba al gobierno vasco a que respetando siempre el marco jurídico vigente se utilizase la contratación pública

y de incorporación laboral a las personas con discapacidad o con especiales dificultades para el acceso del empleo

en la instrucción mencionada y de esa instrucción una parte importante es la que se hace referencia

que es el que va referido a la reserva de contratos para centros especiales de empleo para personas con discapacidad

en el marco de programas de empleo protegido y es en ese epígrafe como bien se ha dicho aquí donde se establecía esa obligación de reserva anual de determinados contratos a empresas de inserción registrada o a centros especiales de empleo y también se recogía como también se ha dicho aquí que el departamento de hacienda tiene que fijar anualmente la cuantía global y sectorial de la referida materia bien

en la comisión de lamegi que precisamente vino a poner de manifiesto la importancia por una parte

que había porque la verdad es que los instrumentos legislativos los tenemos las posibilidades existen y la cuestión es tener voluntad la cuestión es tener voluntar es aplicar lo que ya está recogido en una iniciativa que se puede hacer en una iniciativa legislativa llevarlo a efecto y nosotros es

y en qué términos se cumplía y por otro a instar a ese cumplimiento creo que no sería obligatorio o no tendría

que se demandase desde aquí que se cumpliese una resolución aprobada por el gobierno vasco pero

no ha cumplido este gobierno pero tampoco había cumplido el anterior y esto es desde el dos mil ocho llevamos varios años de incumplimiento y yo creo que si de verdad nos creemos que las cláusulas sociales

ponernos manos a la obra es verdad que la iniciativa viene del año pasado se refería a los presupuestos de este año

vía enmienda de hacer esto efectivo de hacer efectivo que haya esa reserva pero en cualquier caso como decía lo importante puede ser que aparezca la partida pero más importante que aparezca la partida es que exista voluntad de ejecutar esa partida

reservar esa parte y de utilizar de verdad la contratación como un instrumento de inclusión socio laboral y también las reservas como se ha dicho aquí

en las ofertas públicas nosotros la verdad es que la enmienda que se ha firmado recoge lo que la enmienda de transacción lo que nosotros proponíamos y vamos a votar favorablemente a la misma

cámara en bastantes ocasiones sobre la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública este parlamentario ha tenido

estando a favor de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública

diferente normativa justamente esta que se plantea hoy la resolución de dos mil ocho nunca la había citado nunca llegué a tener en cuenta que había un precedente en esta cámara tan antiguo la iniciativa que trae eh bildu hoy se ciñe sobre todo al capítulo cuarto de dicha resolución

por lo tanto me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que hay dos cuestiones una digamos el objeto concreto del propósito de los proponentes y otra sobre el hecho parece ser que incontestable de que es factible introducir cláusulas sociales en la contratación pública lo cual choca

en la que parece ser que esta posibilidad no tenía lugar hablando de otros temas por lo tanto nuestro grupo se congratula en primer término de que estemos todos de acuerdo

hay más que título habilitante para ello para introducir esas cláusulas sociales en la contratación pública sin embargo

es cierto que la legislación existente y me voy a referir en primer lugar a la ley trece barra mil novecientos ochenta y dos

que introdujo ya entonces la obligatoriedad de que en plantillas de más de cincuenta trabajadores administración pública o empresas privadas contrataran el dos por ciento de trabajadores que tuvieran al menos alguna discapacidad esto luego ha sido también derogado y sustituido por el texto refundido de la ley general de derechos de personas con discapacidad e inclusión social

la cuestión alternativa porque como esto no se cumplía se planteó en

centros especiales de empleo personas con discapacidad la verdad es que este hecho a pesar de ser un imperativo legal y

que tiene que ver con la economía social y tiene que ver también como decía el partido popular con las políticas activas de empleo tiene dificultades para ser llevado a cabo en los términos en los que está planteado

porque es verdad estas dificultades no son del gobierno actual sino que es verdad que los gobiernos anteriores también han tenido sus dificultades para poner en marcha

de políticas que desde luego hablan de una sociedad de unas instituciones y de una comunidad que tiene en cuenta esto no solo por cumplimiento de la ley sino también por espíritu por compromiso y por sensibilidad social nosotros estamos lógicamente a favor del acuerdo que se alcanza celebramos que tenga digamos un consenso tan amplio pero queremos llamar la atención sobre el hecho de que aquí se han adoptado algunos acuerdo

claro esta iniciativa referida a la reserva de contratos

choca con el hecho de que aquí se adoptó un acuerdo en su momento por el cual se le pedía al gobierno que habilitase el registro de inscripción para los centros especiales de empleo es decir si en este momento este acuerdo

pero otros que quisieran transformarse en centros especiales de empleo no se pueden inscribir

le pido al gobierno que haga suyo el acuerdo de aquella fecha y que lo ponga en marcha más allá de las justificaciones que ha venido dando luego por otra parte

de cláusulas particulares hay otro acuerdo que se adoptó aquí también en este parlamento que instaba al gobierno a que

se habilita a las comunidades autónomas para que desarrollen el pliego de cláusulas generales el pliego de cláusulas administrativas generales que según

se podría introducir estas y otras cláusulas sociales de las que hemos hablado en su momento para que efectivamente tuvieran ese carácter general

en el incumplimiento o no de otras instituciones aguas abajo

se cumplan porque darían a este que vamos a adoptar mayor sentido mayor

y desde luego con toda la seguridad jurídica celebramos el acuerdo como no puede ser de otra manera y nada más por el momento eskerrik asko

ha tomado como referencia el informe que nosotros también pedimos como

y en ese informe le voy a leer textualmente porque no sé si es el mismo o estamos hablando de dos informes diferentes

contratos participados únicamente por empresas inscritas en los respectivos registros

respuestas disponen sin especificar el carácter de contrato reservado que no se ha contratado con las referidas empresas respecto al análisis concreto de contratos reservados por las diversas entidades consultadas

de contrato reservado en ambos ejercicios dos mil doce dos mil trece

seis de las veintisiete entidades consultadas tres en el ejercicio dos mil doce

asimismo desde el punto de vista de volumen económico osakidetza servicio vasco de salud es la entidad en lo que respecta a mayor volumen económico tal y tal con estos datos no cabe más que concluir que tanto

el mandato efectuado por el parlamento vasco así como la aplicación de la figura del contrato reservado es de una cuantía reducida tanto en los diferentes departamentos como los organismos autónomos y entes públicos de derecho privado por último y visto los datos no cabe más que fomentar el uso de la herramienta de contratación pública como instrumento de lucha contra la exclusión social

ejecutando acciones tendentes a sensibilizar tanto a los órganos gestores como a los servicios de contratación sobre el uso de estas herramientas contractuales el informe sigue

que dice la cantidad que usted se ha referido

a la cuantía de la diputación de gipuzkoa yo no tengo

en el parlamento de gasteiz y estamos haciendo control al gobierno vasco

de gipuzkoa en aras a hondar en la incorporación de cláusulas sociales en la contratación

público y el empleo privado mediante la compra responsable

sí básicamente para decir que esperamos que se cumpla el capítulo cuarto de dicha resolución pero aunque no haya sido objeto de este debate sería deseable que se cumpliera el resto también de la resolución nada más y muchas gracias

la crisis del ébola ha pasado en españa y en euskadi y al parecer no en áfrica occidental aquí parece que esta crisis ya ha pasado y solo nos queda ya afrontar las que vengas después porque van a venir más

de esta decir que vendrán más no es alarmismo

es reconocer que la mayor movilidad aceptar que todos podemos viajar que todos podemos escoger otros lugares para conocer o en los que vivir

a problemas que no hay que eludir sino afrontar y no es ningún problema reconocer esta realidad el problema sería

y que las nuevas decisiones otra vez precipitadas nos lleven a cometer

y la decisión más inmediata es que todo el sistema esté preparado para cualquier eventualidad y la puerta de nuestro sistema son médicos enfermeras

profesionales de las ambulancias los de urgencias y luego podemos hacer todos los protocolos que queramos para atender un caso determinado

pero mientras tanto van a estar acechándonos otros virus

y o otras enfermedades que ya creíamos eliminadas en nuestro entorno y es ahí donde debemos empezar a tomar medidas de la crisis del ébola hemos

por ejemplo que solo quienes estaban sobre el terreno han sido capaces de contener la enfermedad

y de ahí a todo el mundo porque fue médicos sin fronteras y no la organización mundial de la salud la que desde el terreno actuó y sigue actuando

y con ellos con médicos sin fronteras y con los médicos de los lugares afectados otras organizaciones civiles y religiosas que ha habido otras experiencias anteriores de expansión de virus como por ejemplo el de la gripe a en tiempos recientes

para que nuestro sistema de salud y el de los países de nuestro entorno hubiera mejorado su eficacia han sido en este caso de nuevo los profesionales

de la llegada del virus a nuestro entorno los socialistas no vamos aquí a reproducir ahora las críticas que ya se han realizado sobre la gestión de esta crisis

que sabemos que existen tampoco cuestionamos que nuestro sistema sea o no capaz de afrontar una crisis lo que pretendemos es garantizar que los profesionales todos aquellos que hemos señalado que son la puerta de entrada al sistema lo estén

no solo formación periódica sino también adquisición de destrezas de prácticas porque el ébola no ha llegado a euskadi

resistencias que hayan frenado la llegada sencillamente han llegado sospechas pero no llegó el virus y la crisis ya ha pasado pero los profesionales también han señalado y han expresado dudas sobre lo que podía haber pasado en el caso de haberse confirmado

porque más allá del ébola cada día

en urgencias o en las ambulancias los profesionales sanitarios atienden a personas de las que conocen si pueden ser portadores de cualquier enfermedad potencialmente

eso no significa que no estemos muy orgullosos de nuestro sistema sanitario que lo estamos pero eso no significa que esté exento de cometer errores y en lugar de buscar culpables como se ha hecho en madrid con la enfermera contagiada voluntaria

y eso se hace con formación y entrenamiento hay que levantar barreras de protección permanentes y activas hay que ponerse a prueba constantemente como hacen por ejemplo los bomberos que cada día se entrenan y se preparan para situaciones que no han vivido antes y eso lo tienen que hacer

porque no es suficiente decir que aquí seguimos los protocolos de la oms que los seguimos pero hay que decir como décimos hay que estar activos

formación en esta iniciativa hemos logrado

como en el de las enmiendas que se han presentado por parte de todos los grupos un reconocimiento de la necesidad de formación y entrenamiento de todos los profesionales que actúan con los ciudadanos y que deben enfrentarse a situaciones que no pueden conocer de antemano

sino preparación y atención permanente también hace falta que los ciudadanos sean colaboradores activos los socialistas creemos en el principio de la corresponsabilidad

estamos también convencidos de que dependen del buen uso y de la conciencia ciudadana que hagan los ciudadanos para preservar este bien común

creemos que también es necesario facilitar herramientas a los ciudadanos ya se ha hecho mucho camino en esto para conseguir la colaboración ciudadana en la mejora de la utilización del sistema de salud por ejemplo la receta electrónica

las tecnologías que permiten la autogestión de la salud estamos poniendo constantemente al ciudadano en relación con las nuevas tecnologías para que permitan

a él así ahorramos recursos evitamos desplazamientos innecesarios y liberamos tiempo de los profesionales para dedicar a otras tareas

del profesional en esto con todas estas decisiones gana en salud toda la población todavía tenemos retos pendientes como es la conexión eficaz

que nos sirven de antena de eso también tendremos que hablar pero hoy vamos a hablar de los propios trabajadores sanitarios de su necesaria formación continua y que

no solo para garantizar su propia seguridad sino también para saber cómo deben realizar la derivación oportuna de un paciente determinado al lugar adecuado

para evitar cualquier riesgo de transmisión de una enfermedad epidemiológica y hoy en esta cámara hemos alcanzado un amplio consenso y lo hacemos sobre todos sobre lo que sigue ocurriendo con esta enfermedad

lo que queda aún por hacer de forma estructural principalmente la lucha contra el hambre y la desigualdad lo que debemos hacer también aquí para proteger a los profesionales sanitarios y al conjunto de los ciudadanos por eso en estas transacción

colaboren con las organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno contra el ébola y contra la pobreza así como las que deben garantizar la vacuna que evite la mortalidad y mejore la calidad asistencial a los enfermos también reclamamos

planes de formación para los profesionales sanitarios especialmente como ya hemos señalado antes los de atención primaria los de urgencias los de las ambulancias y que estos planes incluyan programas específicos y continuos de prevención

infectocontagiosas de esta forma se va a garantizar la adecuada derivación del paciente la seguridad de los trabajadores y del propio ciudadano

implicado en una situación de emergencias abogamos también por protocolos actualizados

adecuados para desarrollar el trabajo en condiciones optimas todos hemos aprendido de esta crisis todos sabemos que hay que mejorar hay que mejorar

del aislamiento y del tratamiento de los pacientes por fin nuestra enmienda recoge también la necesidad de apostar por una información transparente

en particular en este caso de las enfermedades infectocontagiosas porque ya hemos constatado que el compromiso de los ciudadanos y su implicación con su propia salud y

sin límites y sin tapujos puede ser determinante para evitar

innecesarias como para evitar contagios evitables

presidenta decía y dice la justificación de la iniciativa que parece recomendable a fin de evitar alarmas injustificadas establecer un plan de formación inmediato para los profesionales sanitarios especialmente en urgencias y atención primaria

un posible caso de ébola de otras enfermedades comunes a fin de que estos profesionales puedan adoptar las precauciones que sean precisas y derivar cuanto antes al paciente arbitrado para ello y a partir de ahí la señora roncal nos proponía instar al departamento de salud a que articule a la mayor brevedad un plan de formación específico

cualquier posible caso de ébola y derivarlo a los recursos sanitarios establecidos al efecto distinguiéndolo de cualquier otra enfermedad a fin de ofrecer seguridad a los trabajadores de estos centros y garantías al conjunto de los ciudadanos estábamos de acuerdo con esta iniciativa planteada por la señora

es que haya formación para los profesionales para poder discriminar entre el ébola y otras enfermedades contagiosas menos peligrosas es cierto y ya se viene

afecciones por lo que es fundamental ese primer diagnóstico como única vía para que el paciente posiblemente

rápidamente aislado hasta que se descarte que está o no está infectado por el virus y por lo tanto minimizar

al resto de la población nosotros con nuestra enmienda de totalidad añadíamos un segundo punto incluyendo a otros trabajadores que se pudieran ver en una situación de emergencia algo que ha sido incluida en la

de transacción y en la transaccional finalmente firmada entre una mayoría de grupos el resto de grupos también presentaron en su momento enmiendas interesantes cuyos planteamientos han sido recogidos en esa enmienda de transacción

roncal esta iniciativa se registra el día siete de octubre

al ébola y lo cierto es que si echamos un vistazo a las cosas que se decían en los medios de comunicación y lo que decían

afectados o directamente afectados pues concluimos que efectivamente esta propuesta que finalmente se registró era muy pertinente estas cosas se decían

refuerza la formación del personal pero los sindicatos dudan sobre la eficacia de los protocolos para saber si un protocolo funciona o no hay que enfrentarse a un caso real de ébola y en euskadi hasta ahora solo se han producido falsas alarmas decía jon serrano delegado del sindicato de enfermería de euskadi satse se funciona decía a golpe de prueba y error

y cursos formativos por su parte el portavoz del gobierno señor erkoreka anunciaba que el servicio vasco de salud va a intensificar la formación que imparte a los profesionales los sindicatos no pueden evitar las dudas sobre la eficacia total de los protocolos establecidos alberto martínez delegado de prevención de riesgos laborales

denuncia que entre los profesionales del centro ha faltado información se enteraron de que existía un protocolo cuando tuvieron que enfrentarse a la primera falsa alarma

sin darle ningún tipo de publicidad además fue en ese mismo momento cuando los sanitarios también se enteraron de que basurto es el centro de referencia para casos de ébola

corta con la formación de los sanitarios en realidad se trata de un problema de desconocimiento de todos y las directrices cojean desde arriba

el servicio vasco de salud ha informado y formado en lo que consideran oportuno

hace falta más según roldan hay otras

que carecen de formación para enfrentarse al ébola y la necesitan el día siguiente el día ocho de octubre se decía en los medios de comunicación que sanitarios del hospital bilbaíno

ante el posible ante el peligro real de un caso de ébola las principales quejas de los sanitarios vascos hacen referencia a la falta de material y formación

de ébola no hay material suficiente solo hay unas pocas batas gafas gorros y calzas y además están guardadas bajo llave

en fin estas cosas se decían en aquellos días personal del hospital universitario de donostia revela su inquietud en una concentración a las puertas del centro el sindicato de enfermería insistió en la necesidad de que se revisen todos los protocolos en los servicios de salud

en euskadi por su parte el consejero de salud afirmaba en aquellos días que el gobierno está volcado en poner todos los medios para la atención

se decía también lo decía el propio consejero de salud que el protocolo es el adecuado porque no es distinto al de otros países de la unión europea sin embargo

y formación los profesionales denuncian que no ha habido previsión y se ha actuado sobre la marcha el sindicato de enfermería satse decía miente o vive en otro planeta solo sabemos que el protocolo ha funcionado en los casos de paludismo al día siguiente ela denunciaba que no ha formado a todos los profesionales sobre ébola y lab aseguraba que el personal de ambulancias tampoco ha recibido cursos ni tiene los medios para el traslado de un posible enfermo en fin todo esto demuestra que efectivamente en aquel momento al menos había mucho que mejorar y seguro que todavía hoy hay cosas que mejorar y lo que nosotros reclamamos a través de esa transaccional es que estas cosas se mejoren porque todos tenemos muchos que aprender en esta cuestión nosotros esperamos

la actuación del gobierno y que esta iniciativa parlamentaria sirva para mejorar las cosas de cara al futuro todo lo que tiene que ver con protocolos específicos formación de los profesionales e información a los ciudadanos para que estos también puedan estar tranquilos en relación a qué es lo que hace el gobierno en fin estoy seguro que el consejero el señor darpón así lo pretende y nosotros esperamos que el gobierno

eta momentu honetan gaixotasun hau daukatenekin solidaridad con quienes han padecido y padecen esta enfermedad

que han dejado su tiempo y en algunos casos sus vidas por intentar ayudar a una población que prácticamente no tiene nada como es lo que pasa en áfrica occidental

margaret chan directora general de la organización mundial de la salud

constituía una emergencia de salud pública de importancia

tenían que estar preparados para detectar investigar tratar los posibles casos emitir recomendaciones y formar también a los profesionales

a todos los profesionales y a nuestros profesionales porque creo que

y también recalcar una vez más la idea de que tenemos unos buenos sistemas de salud

que está entre los mejores del mundo y que también por eso están perfectamente preparados para afrontar situaciones complicadas creo que también en esta crisis también y en el caso que hemos tenido

de contagio en españa de los errores se aprende

se superan determinadas circunstancias adversas uno además sale más fortalecido y también me parece importante resaltar la idea de que en estas situaciones de contagio

lo que es muy importante es mantener también la calma estar en permanente contacto con todos los agentes internacionales y los expertos y también la coordinación

e internacional este grupo una vez generado la situación que se generó consideramos también oportuno preguntar al gobierno vasco a través de una batería de preguntas cuál era la situación

sobre los casos de contagio en la comunidad autónoma del país vasco y también pedimos información en relación a las medidas específicas en relación al virus del

preguntábamos concretamente por el contenido del protocolo actual dónde se ha distribuido

dado instrucciones o impartido cursos de formación específicos al personal sanitario

sospechosos y contagiados del virus del ébola también preguntábamos cuántas ambulancias con su correspondiente personal estaban dotadas

del ébola hablábamos también y preguntábamos sobre el material específico de protección con que

del ébola y también que formación e instrucciones específicas han recibido los profesionales para la utilización del material de protección medidas de seguridades adicionales y si también por parte del personal de osakidetza porque sí que vimos unas declaraciones en las que se las medidas adoptadas se consideraban insuficientes preguntábamos expresamente si habían sido solicitadas nuevas medidas de formación y en ese sentido si se iba

de estancia provisional para los pacientes sospechosos hemos recibido respuesta a esta pregunta sí que es cierto que se nos ha proporcionado las normas y recomendaciones de actuación ante casos de sospecha de infección por virus de ébola

con una versión de veintiocho de octubre de dos mil catorce se hace referencia a alguna

mención en nuestra pregunta pero también creemos que algunas otras cuestiones muy concretas tampoco han sido contestadas de forma suficiente en dicha contestación por todo ello quiero decir que esta iniciativa yo creo que es absolutamente pertinente

bilatzeko señalaba que cuando planteamos

la enmienda a la iniciativa del partido socialista consideramos tres cuestiones importantes que tenían que tener su reflejo y tenían que recogerse

de alguna forma así ha sido en gran medida así ha sido mejor dicho pues al final vamos a apoyar la enmienda de transacción acordada

como también a otros profesionales que puedan estar en contacto con personas contagiadas con el virus del ébola y sobre todo que eso se haga con garantías y con tiempo suficiente

este punto ha sido recogido en su integridad y por lo tanto entendemos

y por otra parte también ha sido recogida el aspecto referido a la comunicación que consideramos muy importante que se refuerce la comunicación

del protocolo de actuación en su caso también todas las modificaciones que se lleven acabo de este protocolo

transparente y sin crear alarmismos innecesarios uste dugu hiru puntu hauek agertzen direla egindako

la iniciativa original centraba la cuestión en un plan específico de formación dirigido a profesionales sanitarios y enmarcado en el ámbito de la detección

con las diferentes aportaciones como ya se ha comentado de los grupos parlamentarios a través de sus enmiendas

formación incluimos hoy en el texto transado otros importantes aspectos otros muy importantes aspectos como la colaboración la disponibilidad de medios o la información a la ciudadanía instamos en este texto a

esto en ningún caso quiere decir que el gobierno vasco en general y el departamento de salud en particular haya dejado de colaborar incluir garantizar e informar en ningún momento al contrario más bien significa que continúe en esas acciones de colaboración inclusión de programas específicos y continuos de prevención y detección de enfermedades infecto contagiosas en la garantía

en la información a la ciudadanía y esto es claramente constatable algún portavoz ya ha hablado de los proyectos estructurales recogidos en el punto uno del texto transado con lo cual yo quiero centrarme más en otros tres aspectos claves en primer lugar a mi juicio una cuestión

la constitución de la comisión de actuación y seguimiento del virus de ébola integrada por expertos de diferentes disciplinas como microbiología enfermedades infecciosas cuidados intensivos urgencias pediatría enfermería atención primaria salud laboral y salud pública con una función centrada en realizar un estrecho seguimiento de la situación y coordinar todos los pasos que se están llevando acabo en euskadi para hacer frente a los posibles casos en segundo lugar quizás la parte

más hacía referencia la iniciativa original la formación la divulgación los medios

en lo referido a la formación tanto en los protocolos como en los procedimientos

por un lado el ámbito específico que es el referido a centros y organizaciones relacionadas con el manejo diagnóstico de casos sospechosos es decir emergencias y hospitales de referencia que necesitan un mayor detalle esfuerzo y entrenamiento en este ámbito ya se han realizado las adaptaciones al protocolo además de diversas actividades formativas y de divulgación

previamente definido de actividades formativas y continúan cumpliéndolo por otro lado tenemos el ámbito general

la atención primaria los servicios de urgencias hospitalarias así como los servicios de urgencia hospitalaria del ámbito privado en este ámbito general

formación general el objetivo es dar criterios homogéneos a las organizaciones sanitarias en un proceso de trasmisión de la información y de la formación en cascada

eficaz y rápida en todo lo referido a la implantación de procedimientos de manejo de los pacientes sospechosos además de divulgar información

y científica sobre esta cuestión con dos prioridades claras una rápida detección y gestión de los casos sospechosos

y por otra parte la seguridad de los profesionales sanitarios y no sanitarios que intervienen me gustaría subrayar que no son las primeras intervenciones que se han realizado para divulgar tanto documentos como procedimientos esta acción

hay que enmarcarla en la nueva situación creada a partir del caso positivo de contagio ocurrido en madrid y su repercusión tanto en el ámbito sanitario como en la

las acciones en el ámbito epidemiológico ya se estaban realizando esa preparación continua de la que se nos ha hablado antes ahora

refuerza los mecanismos de prevención formación e información

alcanzar y asegurar una homogeneidad en el manejo de estos pacientes en cualquier punto de nuestro territorio sobre todo teniendo en cuenta la posibilidad de coexistencia

como también apunta la señora roncal en la justificación de su iniciativa el contenido de la formación las materias

está compuesta de tres materias la formación fundamentalmente tres ámbitos el ámbito epidemiológico el ámbito organizativo y el ámbito laboral no me voy a extender en esta cuestión porque está

profundizar la metodología de la formación o la metodología en la formación esa formación en cascada de la que hablábamos

a su ensalada de recortes de prensa señor maneiro metodología en la formación

destinada a trescientos cincuenta personas jefaturas de unidades de atención primaria profesionales de enfermería de las unidades de atención primaria jefaturas de servicio y supervisoras

direcciones médicas direcciones de integración direcciones de enfermería unidades básicas de prevención centros sanitarios privados que tienen servicios de urgencia se programaron

esto no es una improvisación conforme a un calendario

este calendario esta fase inicial del proceso en cascada esta primera fase se cumplió estrictamente una segunda fase a partir del veintisiete de octubre lunes cada organización sanitaria planificó una divulgación también en cascada referida a ella misma de los elementos trabajados

utilizando la misma presentación y documentación planteando un plazo máximo de realización de la acción de dos semanas y este desarrollo de divulgación formativa

a partir del cumplimiento de la fase segunda se pasó a la realización de talleres de formación continua lo que se nos ha comentado aquí ya de la destreza la práctica de la que hoy aquí se ha hablado en resumen un planteamiento de formación y divulgación

eficaz rápido homogéneo y cumplido una tercera cuestión información a la ciudadanía el gobierno está informando a la ciudadanía y no es una afirmación vacía se puede constatar

dirigido a toda la población y está colgado en la web contiene este documento catorce preguntas y respuestas sobre síntomas transmisión y riesgos un documento objetivo claro pero a la vez científico se habilitó también el teléfono del consejo sanitario de osakidetza el novecientos dos punto veinte punto treinta punto veinte

todos los días para parte de nuestra ciudadanía esta información será suficiente otros estarán más ávidos de información estos tienen en la web hasta dieciséis documentos íntegros sobre esta enfermedad como igualmente tienen un gran catálogo de otras enfermedades por otra parte

a esto se les persigue prácticamente con carteles colocados en lugares clave

hasta tres tipos de carteles con mensajes concretos en euskera castellano inglés y francés persiguiendo que cada enfermo esté cuanto antes en manos expertas ese es el principio estar cuanto antes en manos expertas

ha quedado constatado se ha formado y divulgado

y se ha informado y se seguirá haciendo a principios de octubre el consejero reiteraba un mensaje de tranquilidad y confianza en la población y a los profesionales sanitarios basado en la preparación de osakidetza para abordar esta situación hoy

los mecanismos de prevención formación e información podemos concluir que estamos aún más preparados eskerrik asko eskerrik asko